modu zabal batean eta eskerrak hori da lortu duguna nos preocupan las adicciones todas todas las sustancias que causan dependencia pero sobre todo nos preocupan las que a día de hoy pasan desapercibidas las que no están demonizadas ni estigmatizadas las que se perciben como una manera más de socializar y eso es lo que ocurre hoy en día con las apuestas deportivas

adicciones no tenemos tanta información como nos gustaría no tenemos datos concretos sobre los perfiles de la gente que está enfermando está enfermando sí

en una persona enferma crónica porque se rehabilitan

en más de una ocasión hemos dicho que estamos ante un verdadero problema de salud pública y eso es en cierta manera lo que hemos venido

tendremos que analizar los diferentes problemas y habrá que implicarse desde diferentes ámbitos de actuación también

y algunos de estos problemas se solventan con más facilidad que otros por ejemplo la falta de control en cuanto al acceso de los menores de edad a las casas de apuesta o los salones de juego

con mayor control porque los menores de edad entran a este tipo de locales en ocasiones con demasiada facilidad gracias a un estudio que la ocu ha realizado con dos menores de edad en seis ciudades diferentes hemos conocido que bilbao

el acceso a los menores de edad estos dos jóvenes que participaron en este proyecto intentaron apostar en seis locales de bilbao lo consiguieron en tres en la mitad

en la prevención en la reducción de riesgos y daños en las limitaciones y no en las prohibiciones pero en este caso no aquí

es necesaria y esto como decía tiene más fácil solución que otros temas hay que actuar con firmeza porque cuanto más accesible es el juego

de desarrollar una adicción por lo tanto como decíamos en este caso sí control inspección y sanción beste kontu bat da

lortzea no la voy a leer porque es una enmienda transaccional de seis puntos que tienen sobre el escaño pero sí que es cierto que vamos a incidir en los puntos más importantes uno de ellos era ese estudio que solicitábamos sobre todo para tener ese mapa de locales y mapa de

con fiabilidad para saber el perfil conocer el perfil de los usuarios y usuarias de dichos locales conocer su edad conocer sus condiciones socioeconómicas

de esas nuevas adicciones y además poniendo el foco como decíamos que están en situación de exclusión o en riesgo de poder estarlo y en los menores que es lo que en este caso más nos preocupa

tributaria del juego y todo eso una vez hecho ese diagnóstico se llevará a la comisión técnica asesora de juego y al consejo vasco de adicciones donde se podrán hacer las aportaciones

una vez seguidos esos pasos se implementará un plan en base a ese diagnóstico que nos ayudará a revertir la situación que actualmente tenemos

como decía poniendo especial atención a los centros docentes

y desarrollando también que es otra de las cuestiones que pedíamos la ley integral de adicciones eskertzen da talde guztion jarrera

señorías consejero consejera bien

sin sustancias bueno eso ya lo regulamos en la ley a la que ha hecho referencia la señora blanco

de la enmienda de transacción nosotros también incluimos una enmienda parcial

pues entendemos que lo importante será que se haga ese estudio

se hizo también un libro blanco sobre el juego se habló de eso luego ha ido pasando el tiempo y hemos regulado legislado en determinados sentidos pero bueno yo creo que en este momento donde la incidencia

de juego y de nuevas fórmulas de adicciones sin sustancia o de nuevas formas de adicciones imperan o están presentes en nuestra sociedad pues es bueno que se analice y que efectivamente un estudio sobre esa cuestión del juego en euskadi y su incidencia

hay expertos además para hacerlo estamos en un país donde en ese sentido

en la que se puede confiar en hacer un buen análisis de la situación el juego y sus múltiples expresiones

sin sustancia o esas nuevas adicciones el juego a través de lo electrónico a través de la excusa deportiva

que es lo fundamental y que por eso yo creo que llamamos la atención en esta iniciativa

de edad vulnerables por edad o a las franjas de la sociedad vulnerables por la situación socioeconómica que también sabemos que afecta

la enmienda de transacción que han firmado el proponente y los grupos que apoyan al gobierno

vuelvo a decir se ha recogido de alguna manera nuestra enmienda de

la que me referiré en un momentito pero hay una cosa que yo creo que sobra un poco

había que meter análisis de la normativa tributaria

no sé yo muy bien qué análisis hay que hacer en relación con lo tributario en relación con este tema el tributario es un factor

en lo que hay que ver en la repercusión

sobre lo tributario puede exigir lo mínimo entendemos que en un análisis

no entendemos el factor fiscal en la práctica del juego como elemento de análisis aquí eso no lo entendemos

han optado por meter esa vertiente ese factor ahí en el estudio pero bueno no sé todos ustedes tienen grupos en las juntas generales

que cuando el análisis de verdad lo que yo sigo sea un análisis riguroso en relación

de salud o desde las instancias a la que el gobierno vasco le corresponda lo digan lo hagan y lo trasladen

para modificar normativa tributaria hay después de un análisis

y allá o los gobiernos forales o los grupos parlamentarios que apliquen algún tipo de medida tributaria que no sé qué tiene que ver con los temas de prevención de salud pública la verdad

aquí hay que hablar de educación hay que hablar de la información en materias de salud hay que hablar de programas de salud pública de alternativas de ocio de políticas de prevenciones es de lo que hay que hablar pero de normativa tributaria la verdad es que no le entendemos muy bien nosotros hemos presentado una enmienda presentamos una enmienda de adición

con lo que la señora blanco proponía y era una enmienda de adición porque hay motivo para presentarla

del desarrollo de la ley de adicciones si estamos hablando de la incidencia de nuevas adicciones o de adicciones y sustancia en cualquier caso en nuestra sociedad

y tenemos un consejo asesor de adicciones donde hay

experta mucha gente con experiencia mucha gente que trata a personas que caen en las adicciones o mucha gente que trata en la educación

que elabora mucha información

bien se trabaje sobre ese análisis sobre ese informe pero que se hubiese convocado el consejo asesor de adicciones para tratar ese tema es suficientemente relevante y además es en el desarrollo

de adicciones a la que está llamada el consejo asesor de adicciones para asesorarnos a todos a los grupos parlamentarios

se ha pospuesto se ha hecho a un momento posterior nosotros pedíamos que el parlamento vasco se insta al departamento de salud del gobierno vasco a que con carácter previo o sea al carácter previo al informe podríamos ser capaces de negociar

previo simultáneo pero a que convoque al consejo asesor de adicciones organice una sesión monográfica del mismo en relación con las adicciones y sustancia al objeto de recibir qué pues eso

informes de sus miembros pertenecientes a tantas asociaciones instituciones y organizaciones

de su competencia en ese sentido nos hubiese gustado a la par o con carácter previo ese tema parece que queda diferido primero hacer el informe y mandarlo al consejo

nosotros hubiesemos preferido haber oído de primera mano todas esas cuestiones que

está bien claro que supongo que el gobierno tendrá que hacer eso de una u otra materia a las personas que están llamadas al consejo

adicciones se les llamará para participar pero bueno en cualquier caso y en favor del acuerdo votaremos a favor de la iniciativa

hacer un análisis sobre el juego y su incidencia sobre todo en esas franjas de la sociedad más vulnerables como he dicho por edad o por situación socioeconómica las que incide de una manera negativa la mala práctica del juego no queremos de todas maneras que

actitudes clausuradoras o de cerrarlo todo o de prohibirlo todo o de impedir aficiones que pueden tener un cauce normal de expresión con moderación y que además se ligan a factores interesante como el deporte el tiempo libre

un análisis y unas conclusiones clausuradoras vuelvo a decir y de prohibicionistas queremos que el informe tenga unas conclusiones constructivas de soluciones

de adicciones hay personas que pueden aportar de una manera

esperemos que lo hagan en algún momento de la fase de elaboración de este informe

necesitamos ese estudio efectivamente por un déficit de desarrollo de la ley
de adicciones que esperemos que pueda ser compensado por actuaciones como esta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko mahaiburu anderea arratsalde on denoi nos toca debatir hoy sobre una iniciativa

volvemos por tanto a hablar en esta cámara de un fenómeno el del juego y las apuestas deportivas que desde nuestro grupo parlamentario hemos denunciado

una cuestión que preocupa a la ciudadanía y que afecta cada vez más a las jóvenes y adolescentes en euskadi es una evidencia el crecimiento desproporcionado en los últimos tiempos de espacios físicos para apostar

tanto de apuestas deportivas como las de juegos como el póquer o el bingo por nombrar algunos

por todo euskadi las calles y barrios de nuestros municipios se han llenado de casas de apuestas y salones de juego

desde elkarrekin podemos en anteriores intervenciones hemos puesto sobre la mesa datos con los que contamos a día de hoy datos que son escasos

y con ello el número de personas con problemas con la ludopatía en euskadi que asciende ya a cuarenta y tres mil personas y que aumenta especialmente

de dieciocho a veinticinco años los datos apuntan a que las apuestas son el segundo caso de ludopatía por detrás de las máquinas tragaperras y a que los índices de esta adicción

de un seis a un veinticinco por ciento históricamente se constata

el juego y se incrementan las apuestas la razón es simple las dificultades alimentan las ilusiones y el juego produce expectativas de éxito tiene su lógica

la falta de una perspectiva positiva producen un efecto de búsqueda de resultados rápidos

para abandonar las situaciones difíciles de encontrar algo en lo que creer cuando se pierde la confianza en uno mismo y lo dicen los psicólogos y los sociólogos los sectores

infundadas esperanzas se junta la necesidad de hacer algo de dinero la creencia de que pueden ganarlo aprovechando por ejemplo sus conocimientos en un deporte específico y que las empresas regalan cantidades para empezar a jugar

bonos como si fuera droga gratis hasta que se genera la adicción se facilita el juego al poderse apostar en los salones

algo que resulta a todas luces mucho más adictivo incluso que el propio juego presencial el resultado del juego es fabricar ludópatas y entonces

se convierte en un grave problema social las diferentes asociaciones de personas afectadas por el juego

o en proceso de rehabilitación vienen hace tiempo realizando una labor importantísima

sino de trabajo con las personas y las familias afectadas por la ludopatía

el camino que nuestras instituciones han de seguir para garantizar la salud pública de la ciudadanía en lo que a la adicción con los juegos del azar y en apuestas se refiere y están haciendo lo que los gobiernos no están realizando lo cierto es que estamos ante un serio problema social a movilizarse convocando y llevando a cabo protestas en los barrios y municipios de euskadi

asociaciones de vecinos y diversos agentes sociales además es muy sintomático que los lugares donde más crecen sean barrios humildes y con bajo

todos los barrios muchos de los clientes entran en su ruta de poteo de desayuno sin atender a las máquinas del lugar

ya no solo supone jugar hay una reconversión facilitada por la ley

que para los ludópatas puede tener es un aspecto más lúdico

como si fuese un bar y por lo tanto tenemos una imagen más normalizada el negocio está servido y desde los colectivos y asociaciones como ekintza bibe y hasta hacer denuncian que ya han llegado jóvenes menores de entre dieciocho y veinticinco años

así como muchos padres de menores para solicitar ayuda al encontrarse diferentes boletos en las ropas de sus hijos para elkarrekin podemos la situación es grave y es necesario tomar medidas y abordar desde las instituciones medidas planes y campañas que palien el impacto negativo del juego las apuestas y sus consecuencias negativas sobre todo

más vulnerables como son los niños las niñas y las personas jóvenes sin embargo hay que ser conscientes de que para valorar con rigor la situación necesitamos datos actualizados que nos proporcionen una fotografía detallada y exhaustiva

y de las apuestas en euskadi ante la falta de estudios concretos y de un análisis que nos ofrezca una fotografía real de la situación actual del juego y las apuestas deportivas

los partidos de la oposición entre ellos elkarrekin podemos solicitamos la creación de un observatorio del juego como uno de los primeros pasos a dar para realizar de forma periódica encuestas y estudios que nos diesen un punto de partida sobre el que trabajar para abordar esta problemática

esta iniciativa trata tal y como ha explicado la señora blanco de poner en marcha este órgano el observatorio del juego para que funcione y habilite

que nos proporcione un diagnóstico de la situación actual contando además con la participación de los diferentes colectivos y agentes sociales

fiscales también que faciliten la prevención y atención de las consecuencias negativas del juego y las apuestas deportivas

para abordar la situación del juego en euskadi hay mucho trabajo que realizar partiendo de una coordinación interdepartamental y en todos los niveles administrativos en colaboración con las asociaciones y colectivos de afectadas desde las instituciones tenemos que estar a la altura

afrontar eso pasa indiscutiblemente por desarrollar en el menor plazo del tiempo posible

en su totalidad adecuándola y he aquí lo importante a los nuevos

a las nuevas fórmulas y formas de apostar a las que nos enfrentamos además hay que poner en marcha campañas de sensibilización efectivas

que puedan producir las adicciones y sustancias la pedagogía

nos parece una cuestión fundamental bukatzeko eskerrak eman nahi

adostasuna lortzeko gai izan gara sí que nos gustaría hacer una mención a cuestiones de prevención

hay que limitar su presencia en los medios públicos vascos asimismo el gobierno vasco debería comprometerse

no consten como patrocinadores estas empresas y como bien

y mucho trabajo que hacer en lo que respecta a la publicidad

los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad fomentando un modelo de juego responsable

de algunas empresas del sector por lucrase y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable por todo lo expuesto nosotras presentamos una enmienda de adición

porque entendemos que es muy importante el consenso en esta cuestión porque entendemos que además se trataba solo de una cuestión de voluntad política

quiero agradecer la voluntad del resto de representantes de los otros grupos con los que he trabajado la iniciativa

que nos queda por abordar mila esker eskerrik asko garcía

gracias presidenta y buenas tardes la verdad es que queda poco que añadir a lo que ya han precedido en el uso de la palabra además este debate

y es verdad y todos debemos de reconocer que es un tema que preocupa a todos el tema de las adicciones ha cambiado mucho en los últimos tiempos

sin sustancia hay que trabajar en política hay que trabajar en los centros escolares y desde luego también debemos trabajar en las familias porque esto también responde a comportamientos nuevos entre las personas más jóvenes de la sociedad

las fuerzas políticas que estamos en esta cámara compartimos esta preocupación como digo también es una preocupación ciudadana de la que ya pudimos debatir el pasado mes de noviembre

hacer como nos planteaba la portavoz de elkarrekin podemos en euskadi es verdad que ya se han hecho muchas cosas contamos con una ley que es la ley que se aprobó en el año dos mil dieciséis

yo creo que todos reconocemos la incidencia de este tema en la sociedad reconocemos la importancia de la política de prevención y del establecimiento de medidas para intentar

quedarnos al margen de las soluciones junto con la ley y el plan el dieciséis de octubre del dieciocho se aprobó el decreto a través del que se aprueba la construcción del observatorio al que nos referimos de una forma importante en la enmienda transaccional que vamos a votar todos de forma

hoy mismo al mediodía hemos conocido que el gobierno ha anunciado que crea este observatorio para adoptar medidas de prevención y control del juego responsable y además tiene tres objetivos

después de leer la enmienda que todos hemos firmado y que además vamos a votar y después de leer lo que ha podido anunciar hoy

que el gobierno pretende desarrollar es un asunto que nos preocupa a todos muchas veces compartimos el fondo pero nos cuesta llegar a las formas pero en esta ocasión hemos sido capaces de recoger a través de esta enmienda

habíamos planteado a través de nuestras enmiendas unos de totalidad y otros como elkarrekin podemos que planteaba una enmienda de adición por tanto creo que

que las adicciones sin sustancia es una de las lacras del siglo veintiuno las cosas van cambiando y efectivamente nuestros jóvenes

que pueden acabar en adicciones que hace unos años ni nos planteábamos por tanto comparto como acababa la señora portavoz de podemos que queda un largo recorrido por recorrer pero probablemente porque en este tema

una preocupación casi nueva en la política y en la sociedad y estoy seguro viendo el acuerdo alcanzado que a partir de ahora todos los grupos políticos

y efectivamente ese observatorio que hoy anuncia el gobierno cumplirá esos objetivos para conseguir que esta lacra cada día sea menor nada más muchas gracias

comportamentales asociadas al juego cuestión esta de la que ya tuvimos ocasión de debatir como ha comentado la señora rojo

quince de noviembre momentu horretan planteatutako proposamena

desde el convencimiento de que para que se avance de forma real y eficiente

las nuevas formas de juego tenemos que contar con un análisis detallado de las mismas de manera que con mayor y mejor conocimiento se pueda plantear

orientadas a reducir los riesgos asociados a un uso inadecuado y a concienciar y a sensibilizar sobre esta cuestión porque sin duda el auge de la nuevas tecnologías ha implicado un cambio radical en las prácticas de juego

al juego por medios remotos interactivos nos ha introducido una nueva visión respecto del impacto que la actividad del juego tiene entre las personas por la mayor accesibilidad al mismo y por lo que supone de mayor riesgo de adicción

siendo como parece inevitable esta manera de ocio es fundamental saber jugar y apostar de manera responsable

que puede perjudicar tanto la vida de la persona que juega como de las personas de su entorno ez dago zalantzarik jokoak

estamos viendo cómo la proliferación de los juegos de azar combinados con el deporte está generando un importante incremento de las apuestas deportivas y ello a pesar de que en la encuesta de adicciones de euskadi dos mil diecisiete

que más frecuente se realiza seguidos con cierta distancia todavía por la apuestas deportivas si bien es cierto que estas últimas en los últimos cinco años están experimentando un aumento

el hecho de que se convine juego y azar hace que entre la gente joven

de riego que puede llegar a ser peligrosa are gehiago adikzio arazoak

eta gaur egun gazte gehiagori eragiten die por lo tanto es en esto donde hay que poner el foco de atención sin duda y el gobierno vasco es consciente claramente de ello ya se ha hablado aquí pero bueno reiteramos porque es importante tenemos una

de atención integral de adicciones y drogodependencias un nuevo plan de adicciones

una buena normativa específica de juego muy detallada que es además a la que se remite la ley de adicciones en cuanto a juego se refiere por tanto no voy a repetir todo aquello que también comenté o indiqué en mi intervención pasada

desde hace tiempo con normativa y con instrumentos para actuar e intervenir en el ámbito de las adicciones comportamentales como el juego lo cual deja muy a las claras

sin embargo es cierto que no podemos obviar que están surgiendo unas nuevas realidades nuevos problemas a los que es necesario

una realidad que requiere de pasos orientados a la búsqueda de alternativas para abordarla desde diferentes ámbitos como el de la prevención la sensibilización

en euskadi es necesario tener un diagnóstico de la realidad tener información suficiente sobre este fenómeno tan complejo que sirva de base para poder implantar medidas específicas porque en definitiva un diagnóstico preciso del problema será básico para tomar las medidas más acertadas posibles

el camino y así lo mantuvimos en su momento y lo defendemos ahora como dijimos y reiteramos

por esta razón la enmienda de totalidad propuesta por nuestro grupo junto con el grupo socialista

y en la que se instaba al gobierno a elaborar un estudio sobre la situación del juego

y planteamos además que este estudio se realice a través del observatorio vasco de juego recientemente creado y que precisamente tiene como finalidad el estudio y análisis permanente del juego en euskadi

vasco con personas expertas en áreas temáticas relacionadas con el juego o

es el vehículo adecuado para realizar este estudio es un planteamiento coherente con los pasos que desde el propio gobierno se están dando conscientes de la necesidad de estar de forma permanente atentos y pendientes a la evolución del juego para lo cual precisamente ha creado un observatorio a este fin por tanto y también se ha comentado lo ha comentado ya la señora rojo casualmente hoy mismo

se ha realizado la primera reunión de este observatorio vasco de juego con lo cual queda constituido formalmente y en esta línea creemos que es lógico canalizar a través del mismo

que se deberá de remitir a los órganos de participación en el ámbito de juego y adicciones en euskadi y a partir de las conclusiones de este estudio

y a pesar de que tenemos nuestras diferencias hemos conseguido llegar a un consenso a un acuerdo que además es un texto que complementa al que fue aprobado ya el pasado quince de noviembre al que he hecho ya referencia incorporando nuevas cuestiones que no voy a repetir porque se han ya explicado aquí no voy a alargar más en este tema pero desde luego

importante así que termino agradeciendo la disposición de los grupos para llegar a este acuerdo

todos tenemos una importante preocupación y desde luego en la que hay que avanzar y mejor si es desde el consenso

de la constitución de ese observatorio vasco del juego creemos que por una maravillosa alineación de los

es una satisfacción que ese observatorio esté creado porque eso nos ayudará a que lo que estamos aquí aprobando hoy se realice bastante antes y solamente para decirle al señor barrio que es cierto que la importancia que le daba al consejo vasco de adicciones

proposición no de ley nos parecía adecuada y sí que es cierto que ahora se va a proponer esa reunión una vez hecho el

y que conoce muy bien este ámbito y que pueden hacer unas aportaciones interesantes

en un principio se planteaba hacerlo antes de ese análisis y ahora lo que se plantea es hacerlo antes de ese plan de acción con el análisis en la mano con lo cual también creemos
que es bueno que el consejo tenga mesedez isiltasuna eskerrik asko también creemos que el consejo

las aportaciones de una manera mucho más solvente en cualquier caso de nuevo agradecer a todos los grupos la unanimidad en este punto besterik ez eskerrik asko

una pequeña puntualización señora blanco ha habido por suerte una confluencia de los astros porque casualmente la convocatoria del observatorio del juego estaba realizada con anterioridad

consejero jon darpón compañeras y compañeros parlamentarios

brevemente porque hay un acuerdo de todos los grupos en la proposición no de ley que voy a presentar una reflexión y una preocupación sobre la situación de la atención primaria en osakidetza en estos momentos

en estas horas de la tarde en este tema tan relevante y que suscita tanto acuerdo al señor lehendakari y al consejero de salud

agradecer a las compañeras parlamentarias laura garrido eva blanco y natalia rojo

pues su colaboración en que salga adelante un acuerdo

situación crítica en la que estamos alcanzar el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales en todo ser humano

que todas las personas incluidas las marginadas y vulnerables deben tener acceso a los servicios de salud que sean de buena calidad

y que no tengan dificultades financieras la atención primaria de salud es el enfoque más eficiente

para mejorar la salud lo que le convierte en un elemento esencial en cualquier sistema de salud la atención primaria pues es la atención sanitaria esencial en cualquier sistema de salud pues bien desde el inicio de la crisis social y económica del dos mil ocho el presupuesto promedio dedicado a la atención primaria en nuestro país que como sabéis tiene

el departamento de salud ha disminuido en más de cinco puntos

porque sabéis como yo que no están desagregadas las cifras de los presupuestos

la inversión y el gasto corriente en la atención especializada hospitalaria sin embargo ha aumentado asimismo han aumentado las inversiones y gastos de la gente del bolsillo de la gente

en relación con inversión y gasto que el sector público ha hecho

hoy las demandas sociales y profesionales se multiplican

de la atención primaria de salud en andalucía en cataluña en burgos en galicia sino que ya más de seiscientos profesionales vascos han convocado huelga en los centros de salud de osakidetza para los días quince de marzo doce de abril y diecisiete de mayo y han abierto un proceso negociador

arnasberritzen a finales de dos mil diecisiete apoyada por organizaciones como osatzen sociedad en medicina comunitaria del país vasco y osalde asociación por el derecho a la salud entre otras

y no pocas plataformas y asociaciones vecinales cansados del aumento de cargas de trabajo por falta de sustituciones

por los contratos precarios y desincentivadores a veces de horas cansados de la disminución de tiempo por paciente que alteraba la calidad de la atención

y profesionales de enfermería y en fin cansados de la falta

de pediatras y otros profesionales que alteraban las sustituciones adecuadas por los procesos de jubilación estas son las consecuencias de no tomar decisiones a tiempo

o se han presentado ya mociones en varios ayuntamientos de euskadi

efectivamente por fin después de seis años de gestión

asunto que saludamos por fin después de seis años de gestión de los dirigentes actuales del departamento de salud

estrategia para la atención primaria de salud que nos lo presentó el señor consejero

y que se nos presentará oficialmente próximamente en la comisión de salud llegó hace dos días aproximadamente certificado para su debate y búsqueda de amplio consenso

una planificación de recursos adecuada y un plan de despliegue de nuevas contrataciones de profesionales en los centros de salud según necesidades y desigualdades en salud detectadas en los procesos de atención pendientes de una estimación negociada más ajustada hay propuestas autorizadas que consideren que se debe contratar

más de cien profesionales en los tres territorios de diversos perfiles

fisioterapeutas etcétera con contratos de tres años mínimos tanto en plazas vacantes como en bolsas de sustituciones estimamos una prioridad de la dirección general de osakidetza y mencionar

para recuperar la calidad de la atención al menos diez minutos por paciente para disminuir las cargas de trabajo profesionales para eliminar las listas de espera no más de cuarenta y ocho horas en la atención primaria y permitir espacios de tiempo de trabajo que permitan valga la redundancia

en los centros escolares en los centros de trabajo y en los domicilios la investigación en atención primaria y las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad asimismo tiene una importancia esencial incentivar los contratos laborales y sus itinerarios para captar profesionales impidiendo que se vayan al extranjero

no prioritarios para el conjunto del sistema de salud el señor consejero

sin duda tenía otras prioridades el problema es hasta cuándo otras prioridades van a intentar cortar las medidas que ya se contemplan en el documento de estrategia para la atención primaria de euskadi hasta el colapso del sistema

sabemos que se está desarrollando un osakidetza más caro que se lo come todo aumenten el presupuesto se lo come todo osakidetza dos millónes

menos sostenible y menos equitativo le proponemos le pedimos le rogamos que priorice la salud pública y la atención primaria

más equitativo más sostenible y más eficaz

no pueden más ya lo han dicho en varios titulares y van a ir a la calle

y cuantos colaboran directa o indirectamente con la descapitalización de la atención primaria de salud eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

asistencial esencial y decía que actualmente además la atención primaria

población con la atención a enfermedades crónicas a la cronicidad a enfermos pluripatológicos y también hay que destacar el importante

de la salud ello obliga a impulsar cambios en el modelo organizativo y de gestión de la atención primaria tal y como lo teníamos configurado

bideratzea por lo tanto es necesario potenciar y reforzar los recursos de la atención primaria cuando hablamos de reforzar estos recursos hablamos de recursos

y recursos económicos dispositivos asistenciales adecuados y sobre todo dispositivos como son los centros de salud y los

a nadie se le escapa la capacidad resolutiva de la atención primaria

de los pacientes a otros profesionales a otros circuitos sanitarios y cómo los profesionales de atención primaria

los usuarios y los pacientes que acudimos a la atención primaria por eso se dice que

representa un auténtico rol preventivo y activo también vinculado estrechamente a esa capacidad

cuando hablamos de reforzar el modelo de atención primaria hablamos de algunas cuestiones que creo que señalar y hay que resaltar expresamente como es la coordinación como es el reemplazo de los profesionales que es una cuestión a los que nosotros hacíamos referencia en nuestra enmienda

el tema de las sustituciones problemas que tenemos específicamente en momentos

que se traducen en problemas que se enquistan como tienen que ver en determinados periodos vacacionales los problemas que hay para sustituir a las profesionales en vacaciones

la necesidad de fortalecer la atención pediátrica y hacer también una especial apuesta por el modelo de atención

cuando hablamos de escasez de profesionales y voy acabando si bien es un problema generalizado

muy conscientes en euskadi del problema que tenemos con

población y en ese sentido todo el abordaje de las enfermedades crónicas a las que me he referido anteriormente y esa escasez de profesionales en el ámbito sociosanitario

indudablemente se va a agravar en los próximos años

analizar de una vez por todas la excesiva burocratización de la atención primaria incidir en aspectos

sanitaria la atención primaria así como una redefinición

primaria con una redefinición de sus funciones así como un impulso también de las consultas a domicilio porque si hablamos del impacto de las enfermedades crónicas todos sabemos también que las personas mayores en la medida de lo posible también desean de ser tratadas en el entorno del domicilio y todo esto sin olvidar la sostenibilidad del sistema sanitario que hay que adoptar medidas que hagan eficaz eficiente y sostenible

de salud por lo tanto nosotros satisfechos con la enmienda acordada nik uste dut gure eskaera eta profesionalen eskaera zehatza agertzen dela eta

gaude pero sí que es cierto que aunque algunas cuestiones y este debate y estamos viendo movilizaciones en el conjunto de españa no solo en el país vasco

que hay que resaltarla que es reseñable de la capacidad económica que tenemos en el país vasco en el país vasco destinamos

por habitante se realiza un importante esfuerzo en la consignación presupuestaria en los presupuestos de sanidad y eso también

que se adopten medidas efectivas para paliar todos aquellos déficits que en este momento presenta la atención primaria y que además está siendo

analizada con un momento de reflexión también con propuestas concretas

definitiva también cómo se pone en marcha el consejo asesor en materia de atención primaria es un consejo nuevo hasta ahora solo

al gobierno vasco es una posición activa y adopción de medidas concretas en el ámbito obviamente que le corresponde

todas aquellas deficiencias que actualmente presenta la atención primaria y sobre todo para afrontar los retos de futuro que tenemos que no son pocos nada más muchas gracias eskerrik asko

y como no es una estrategia demasiado consensuada pues hay que hacer

entre otros pues que varios profesionales se están movilizando en la calle lo estamos viendo aunque desde luego no es el aspecto que ha nosotras más nos preocupa o que solo nos preocupa como hemos dicho la organización de recursos

es fundamental no solo por la motivación y la satisfacción de todos y cada uno de los profesionales que trabajan en este ámbito sino porque eso sin duda revierte en la atención al paciente pues no olvidemos que es precisamente el paciente el que tiene que encontrarse en el centro de todas las políticas en salud

que incidan en la prevención y en el empoderamiento del paciente paciente que en ningún caso se vea afectado por el exceso de burocracia por las listas de espera

que son ajenas a sus intereses y a sus necesidades eta hori esanda elkarrekin podemosek aurkeztutako jatorrizko

pero nosotras no somos tan optimistas

parece que los tres puntos que se han acordado y que nosotras también hemos firmado muy declarativa y se le insta al gobierno a hacer cosas que en realidad va a hacer

segundo que cuente con la participación del consejo asesor de atención primaria faltaría más que no contase con ese consejo persiguiendo mayor consenso eso sí es importante a nuestro punto de vista pero como digo algo que el gobierno tiene previsto hacer y luego en base a ese

primaria creemos que también ese es el objetivo del gobierno debería de ser por lo tanto estamos instando mediante una enmienda transaccional algo que creo que el gobierno tenía en mente hacer vamos a ser sinceros hemos firmado lo que hemos firmado yo no creo que sea una enmienda transaccional para tirar cohetes señora garrido me parece bastante declarativa

no sé si es para echar cohetes o no lo que es verdad es que esta enmienda transaccional responde a un compromiso que tenía el gobierno de la estrategia para la atención primaria de euskadi y al final lo que viene recogiendo es lo que todos los partidos políticos hemos propuesto que recoja la enmienda es decir porque quizás si hubiéramos propuesto otras cosas pues recogería otras cosas pero

el texto lo que hace es una fusión un poco yo creo que de todos es verdad que si cada partido político hubiéramos escrito nuestro propio texto y solo hubiera sido ese pues probablemente el nivel de ambición de unos iría en una línea en otros de otra en otros de otra pero bueno al final el juego político está en ser capaces de llegar al texto que hemos y desde luego dar una oportunidad al gobierno para que en esa comisión cuando nos presente la estrategia de atención primaria poder escuchar todo aquello que va a recoger y efectivamente ver sí es ahí donde podemos ser más o menos exigentes con el mismo porque es justo reconocer que esta estrategia se ha venido trabajando durante más de un año en este debate ha participado no solo el consejo asesor sino han participado sectores de todas las osi de osakidetza y los colegios profesionales de médicos

que probablemente todos han dejado pelos en la gatera pero que efectivamente se ha trabajado con aquellos sectores que desde luego tienen mucho que aportar en lo que tiene que ver con la política sanitaria en la atención primaria como han dicho los anteriores portavoces es verdad que la atención primaria hoy

hay quienes no están de acuerdo con lo que se está haciendo y desde luego tienen su derecho de protesta de huelga y de plantear

pero es verdad que es un eslabón fundamental en el desarrollo de la política sanitaria y también es ese que es más cercano al ciudadano comparto con la señora blanco que efectivamente el paciente

en la primera línea de la política sanitaria de euskadi y nos parece importante por lo tanto no solo hay que hablar de las demandas de los médicos que sí porque son los profesionales que desarrollan

son los pacientes y deben ser escuchados deben de tener el tiempo suficiente para ser atendidos

trabajando porque todo eso tenga las mejoras necesarias creo que poco más se puede añadir de lo que han dicho anteriormente si nos centramos únicamente en lo que nos planteaba el señor uria yo voy a decir una única cosa no pretendo abrir el debate porque hay unanimidad y creo que es justo no

me parece injusto algunas afirmaciones que se hacen en lo que tiene que ver con los presupuestos porque cuando el presupuesto es muy alto porque el presupuesto es muy alto y el departamento se come todo lo que tiene cuando al departamento le bajamos el presupuesto es porque no se le da importancia a ese departamento

me parece que ese tipo de afirmaciones no sé yo creo que estos presupuestos los que no han salido adelante y que sí presentó el gobierno creo que eran más realistas que los anteriores creo que este gobierno había hecho un esfuerzo importante por apuntalar determinadas políticas para continuar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos

en ese proyecto de presupuestos que en otros casos se hacían pero no estaban consignados por tanto creo que el departamento de salud del gobierno vasco es el que más dinero tiene del resto del gobierno porque se considera una prioridad fundamental poder desarrollar todo lo que tiene que ver con las políticas de salud también

en muchas comarcas de euskadi y probablemente la atención primaria se le podría dar más como se le podría dar más a los hospitales a las farmacias a todo

por tanto para eso están las negociaciones presupuestarias para eso están las votaciones en el pleno de los presupuestos y lo que tenemos hoy es una atención primaria por la que este gobierno va a trabajar

y desde luego sí creo que se ha trabajado por el consenso y por la mejora de las condiciones de estos médicos siempre pensando en los pacientes como receptores de la política sanitaria

con una afirmación la atención primaria ha jugado un papel fundamental en el sistema sanitario vasco y ha desarrollado funciones imprescindibles para proporcionar a todas las personas que viene a euskadi

de calidad una afirmación que como no se podría esperar otra es normal o lógica la argumentación de un parlamentario que defienda a su gobierno a este gobierno

hice un ejercicio de memoria el escenario

de los primeros treinta años de mi vida fue derio qué imagen guardo referida

pues guardo dos imágenes una imagen en blanco y negro

y un único médico don juan y la consulta del practicante encima del bar jose mari junto a las barreras cerca de la estación y luego tengo una foto que es en color el centro de salud en el entorno de la reforma de los años ochenta o yo diría de la revolución del sistema de los años

con lo cual ahora sí que diría que efectivamente la atención primaria ha jugado un papel fundamental en el sistema sanitario vasco y así nos lo dicen los principales indicadores de salud que constatan que nuestra esperanza de vida

los ochenta y tres coma dos años tres años por encima de cualquier otro ciudadano o ciudadana europea y junto a la esperanza de vida en japón por ejemplo en la cabeza del nivel mundial

que supera la media europea y es una de las más altas del continente unos resultados que no cabe atribuir en exclusivas sin duda al sistema sanitario pero en los que este tiene mucho que ver gracias además

económica mantenida a lo largo de los años por los sucesivos gobiernos a la labor clave de los y las profesionales sanitarios un logro por tanto de toda nuestra sociedad

fortalezas del modelo vasco de sanidad pública su accesibilidad

y ciento noventa y seis consultorios repartidos en los tres territorios históricos y que son además la puerta de entrada al sistema otra fortaleza

que conforman el nivel de atención primaria otra fortaleza la capacidad de resolución que tienen esos profesionales

especialistas capaces de resolver directamente la mayor parte de los problemas o de orientarlos al recurso sanitario que necesitemos y que

en un nivel donde la universalidad se manifiesta en toda su extensión sin embargo como ya se ha apuntado

los problemas del éxito en gran medida y de una bajada notable de las tasas de natalidad esto no tanto está transformando nuestra

hacia el envejecimiento eso está modificando el patrón epidemiológico al que el sistema sanitario debe dar respuesta encontramos la cronicidad la descendencia tenemos que hablar como ha

hay que reconocer yo creo que todos reconocemos que durante los últimos años la administración vasca viene trabajando precisamente en adaptar el sistema sanitario a las nuevas realidades

de la sociedad un ejemplo claro es la transformación del mapa sanitario vasco en trece osi o el sustancial avance en la coordinación

por otra parte el recambio generacional de los profesionales es otra realidad a afrontar por supuesto que hay retos

pero euskadi también presenta una situación más favorable que otros lugares

con promedios de médicos de familia enfermeros y enfermeras pediatras

con medias más altas de estos profesionales

en atención primaria cuando hablábamos de recursos

en una década se ha duplicado de dos mil doscientos

una potente herramienta para adaptarse a esos retos para avanzar por encima de esos retos las líneas estratégicas

esta potente herramienta cuál es su objetivo último

tres diría tres primero prestigiar prestigiar la atención primaria en segundo lugar fortalecerla fortalecer su papel el de la atención primaria y en tercer lugar adaptar el modelo de atención primaria

siempre desde la consideración de la salud como derecho fundamental el consejero de salud decía no hace mucho se trata de una hoja de ruta encaminada a preservar decía el buen modelo de atención primaria que la sociedad vasca

y a mejorarlo para dar respuesta a los desafíos de un nuevo tiempo y sobre todo a las necesidades de las personas que los protagonizarán

se definen esas siete líneas estratégicas no las voy a recordar son muy interesantes no las voy a recordar porque en breve nos lo recordará el consejero por eso nosotros como parlamento

impulso al gobierno traíamos esta iniciativa o la traía el señor uria pero lo que podemos constatar en cualquier caso es que el gobierno ya estaba en marcha

el gobierno ya estaba en marcha ya estaba en marcha ya estaba impulsado por él mismo autopropulsado el gobierno está activado en esta cuestión ha andado tarde el gobierno

lleva mucho tiempo trabajando en esto no ha andado tarde señor uria no ha andado tarde me alegro de haber llegado

o que se haya llegado a este acuerdo por unanimidad y yo realmente como decía la señora rojo

devaluar este acuerdo haciendo un comentario señora blanco del tipo bueno

acordado en primer lugar o como primer punto

bueno en el primer punto no hemos acordado eso señora blanco en el primer punto hemos acordado que el consejero venga a presentar la estrategia y no solo eso

y que nos traiga una definición que nos traiga un diagnóstico que establezca la dotación presupuestaria necesaria

y la planificación de recursos necesarios eso es algo más de que venga el consejero vendrá el consejero pero vendrá con unos deberes

no que venga el consejero no para mí yo no voy a echar cohetes pero para mí algo muy importante y fundamentalmente este acuerdo lo considero importante porque

lo que el fin último es la motivación y la satisfacción

pero no solo eso como también decía la señora rojo sino la cobertura de las necesidades de las y los pacientes siempre con el objetivo de perseguir esa mejora constante mejora constante en calidad en equidad

eskerrik asko berriro mahai buru andrea eserlekutik señor aiartza creo que me ha entendido perfectamente en ningún caso he dicho yo que el consejero

pero creo que me ha entendido perfectamente cuando he dicho que el consejero venga él también me ha entendido porque el consejero tiene pedido ya la comparecencia

y evidentemente vendrá la comisión a explicar ese plan

esa estriega de atención primaria que es para lo que ha pedido esa comparecencia

jocosa bueno pues también le agradezco eskerrik asko eskerrik asko blanco